desde aquel primer momento en que hasta costaba hacerse con mascarillas y en que pensábamos que solo envueltos en gel

hasta hoy muchas cosas han pasado mucho hemos sabido y aprendido y muchas decisiones han tenido que tomarse para intentar minimizar el daño que en todos los aspectos el covid provocaba por cierto

diseñado para hacer frente a la primera ola pandémica la más compleja de todas

comunicación en innovación en el congreso nacional de hospitales

ya en el actual momento a ver si van permitiendo

todos los indicadores de la pandemia presentan una evolución claramente positiva esta misma tendencia se está produciendo también en nuestro entorno las medidas aprobadas en el último decreto tras el consejo asesor del labi

el curso presencial se ha iniciado con normalidad en los centros escolares

y también ha sido positivo el balance del sector turístico este verano bilakaera positibo hori sendotzen ari dela dirudi eta

la comisión científico técnica analiza la posibilidad de adecuación de las medidas a las previsiones para el nivel uno que establece

en este contexto y dado que estamos cumpliendo los objetivos he convocado para este próximo martes el consejo asesor del labi seguiremos analizando la evolución epidemiológica y ojalá en función de que en estos días prosigamos con la evaluación

podamos abordar el decreto que establezca el fin de la situación de emergencia sanitaria la indudable mejoría de la situación no disipa en cualquier caso todas las incertidumbres y amenazas latentes por este motivo

pandemia global concluya es necesario seguir manteniendo el análisis epidemiológico diario

y observar la evolución de las variantes del virus estamos realizando un gran esfuerzo durante dieciocho meses mantengamos la prudencia y las medidas de protección mascarilla distancia evitar aglomeraciones y ser solidarios en el comportamiento preventivo

a la salud de las personas de cada persona debemos seguir cumpliendo

y guiándonos por los criterios de prudencia compromiso corresponsabilidad y equilibrio garai berri bat hasteko atarian egon gaitezke txertaketa prozesua burutu behar dugu

pacto de ejercicio de soberanía compartida no desprecie estos conceptos todos son importantes un acuerdo entre quienes se reconocen y respetan para tomar decisiones institucionales y políticas desde un reconocimiento de la capacidad singular de euskadi para la toma de decisiones

pueda imponer sus decisiones de forma unilateral las instituciones tenemos la responsabilidad de liderar un pacto político e institucional

y mirar al futuro ahora precisamente ahora que estamos ya a las puertas de superar esta pandemia y dejar atrás estos largos meses duros y difíciles toca también hacer balance de la respuesta que han dado nuestros servicios públicos a la ciudadanía en una situación tan delicada

que la unidad de acción es fundamental que la responsabilidad colectiva y la colaboración entre instituciones es más necesaria que nunca y que los servicios públicos son un bien y casi más que un bien un derecho en sí mismos sin duda es el momento

de modernizarlos adaptándolos a los tiempos que vienen haciendo posible que sean esa herramienta indispensable para dotar de la mayor calidad de vida a las personas

a las medidas necesidades y circunstancias que durante toda esta pandemia han ido produciéndose interrumpiendo su servicio ante un confinamiento global garantizando unos servicios mínimos para que la ciudadanía que prestaba servicios de primera necesidad al resto

adaptando los horarios y líneas a la afluencia de usuarios eliminando los servicios especiales ante la ausencia de eventos multitudinarios pero a su vez

con las normas establecidas por las autoridades sanitarias un periodo de adaptación continua dando el mejor servicio posible sin duda es buen momento para mirar atrás pero única y exclusivamente para hacer balance y tomar las medidas oportunas para impulsar los servicios y para afrontar el futuro con plenas garantías por eso señor consejero yo le pregunto cuál ha sido la evolución del número de pasajeros de los servicios operados por euskotren

efectivamente el transporte público al igual que otros muchos sectores se ha visto muy afectado

registrándose descensos muy significativos en el número de viajeros sobre todo dos mil veinte un año en que las restricciones a la movilidad han sido muy acusadas

dos mil veintiuno se está empezando a apreciar una tendencia a la recuperación hacia niveles de utilización anteriores a la covid

de hecho hasta este pasado agosto el número de viajeros transportados a lo largo de dos mil veintiuno en el conjunto de los servicios operados por euskotren se ha situado en diecinueve millónes

son tres millónes y medio más que los pasajeros transportados en el mismo periodo en el año dos mil veinte

que los que hubo en el año dos mil diecinueve por servicios observamos una progresiva mejora en todos los datos de utilización en lo que llevamos de año se ha contabilizado doce coma uno millónes de personas viajeras en ferrocarril y esto supone una recuperación de un veinte por ciento de pasajeros respecto

de niveles precovid lo mismo ocurre en los servicios de tranvía tanto en bilbao como en vitoria gasteiz donde también se observa una tendencia

durante el año pasado en plena pandemia la utilización del tranvía de bilbao descendió hasta el cincuenta por ciento y la del tranvía de vitoria gasteiz al cincuenta y cinco pues bien

dos mil veintiuno se han ido mejorando esos datos con un incremento en la utilización del quince y del veinte por ciento respectivamente y a día de hoy en bilbao se está circulando al sesenta y cinco por ciento

prepandemia también hay una mejoría

que este año ha recuperado ya el setenta y siete por ciento de las personas viajeras me gustaría reseñar también que un año y medio después en servicios especiales el domingo diecinueve de septiembre se tomaron los refuerzos específicos para los

al incrementarse el aforo hasta el sesenta por ciento desde euskotren se decidió ofrecer

prepandemia con el objetivo de facilitar a la afición que pudiera distribuirse en los trenes

las concentraciones en la medida de lo posible por otra parte señalar que ya se circula al cien por ciento de la capacidad con todos los servicios operativos

siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias

sigan produciéndose desde euskotren vamos a estar muy atentos a las decisiones que se vayan decretando en función de esta evolución y continuaremos

siga recuperando e incrementando usuarios de forma progresiva porque el gobierno

a favor del transporte público como eje vertebrador de la movilidad en euskadi transporte sostenible y de calidad al alcance de toda la ciudadanía

jaime tapia a principios de este mes que el objetivo es conseguir que el cuarenta por ciento de las personas presas estén en régimen de semilibertad cómo se hace eso para eso hacen falta recursos

efectivamente hacen falta recursos y hasta ahora los únicos recursos que conocemos

previsto para subvencionar proyectos de inclusión socio laboral está bien pero qué más qué más se va a hacer existe también y también quisiera llamar la atención en las bases para la implantación de modelos penitenciarios de abril de dos mil veintiuno se hablaba

en relativo a las hijas e hijos de mujeres privadas de libertad que se atenderá al interés superior del menor con la privación de libertad de sus madres

estas cuestiones son cosas que necesitamos saber para hacer una correcta una buena política penitenciaria en definitiva la resocialización

es el objetivo principal de la política penitenciaria yo aquí sí quisiera hacer valer la experiencia en la cárcel de navarra que

en septiembre hay un ciclo de cine sobre reinserción y justicia restaurativa en la cárcel de iruña

ha habido nada más y nada menos que doscientos solicitudes de encuentros restaurativos bukatzeko har dezagun aukera bezala

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea aukera erabili duzu hainbat aldiz y efectivamente este parlamento vasco acaba de aprobar la creación por ley de aukerak
también con su apoyo la agencia vasca de reinserción social es la herramienta para avanzar en la gestión y en la organización penitenciaria los objetivos son mejorar las posibilidades de resocialización de las personas penadas

con una menor reincidencia por otra parte hemos establecido las relaciones de coordinación entre los departamentos implicados educación seguridad salud o trabajo con igualdad justicia y políticas sociales hemos puesto en marcha la colaboración con las instituciones que prestan servicios

o las confesiones religiosas también estamos elaborando un convenio con eudel

en beneficio de la comunidad vamos a priorizar la inclusión de la perspectiva de género y la situación de las mujeres en las cárceles la protección de las hijas o hijos de las personas penadas los problemas de salud mental los programas de justicia restaurativa al que usted ha hecho referencia la integración laboral

el proyecto de presupuestos dos mil veintidós contemplará el compromiso de gasto preciso para implantar nuestra hoja de ruta y espero que todas estas preocupaciones que usted ha manifestado sean incluidas también en el proyecto de presupuestos y cuenten con su apoyo en todo caso

esa hoja de ruta la que fije también las bases para el desarrollo del modelo penitenciario vasco conocen esta hoja de ruta que ha sido presentada en esta cámara beraz

desde el comienzo de la pandemia su gobierno ha recibido importantes varapalos de la justicia por no proteger adecuadamente a ertzainas sanitarios frente a la covid diecinueve por aforos en campos de fútbol

es preocupante la incapacidad de este gobierno para justificar sus decisiones y más preocupante su reacción ante sentencias contrarias ni una sola reflexión rectificación

sin recurrir las decisiones que tanto critican es decir sin argumentos jurídicos capaces de cuestionar esas decisiones

hablando de respeto sí pero exigiendo jueces de aquí con sensibilidad de país las resoluciones a ustedes

las resoluciones han sido tachadas de antiautonómicas o de desprecio a la ciencia los ataques personales a los jueces han sido vergonzantes

diciendo que desconocen las cuestiones sobre las que se pronuncian o que se exceden en sus competencias y se ha afirmado en fin que los vascos vemos a los jueces y al poder judicial

arrazoia ez badiete ematen pero permítame que le diga que para ustedes sensibilidad de país significa sumisión al gobierno vasco

sensibilidad de país significa jueces con eusko label o un que se vayan judicial y yo me pregunto lehendakari

amparo a los vascos frente a decisiones de su gobierno dar la razón

es carecer de sensibilidad de país reconocer la desprotección de los sanitarios es desconocer los temas sobre los que se pronuncian los jueces da la sensación que cargan contra jueces porque para ustedes que otros vascos acudan a los tribunales y ganen

por eso le pregunto valora como adecuadas en un estado de derecho las reacciones de su gobierno y su partido ante las sucesivas sentencias desfavorables de los tribunales

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz me gustaría que cuando se refiera a mí o al gobierno en su caso precisara usted

zuen ustedes que lo precisaran y en todo caso yo le voy a hacer una precisión

judiciales dictadas por la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia del país vasco no son sentencias son autos que no han entrado al fondo de la cuestión y la sala ha resuelto en plazos muy breves peticiones de adopción de medidas cautelares

le podría hablar desde cuándo estamos esperando también sentencias dena den zuzenbidezko estatu batean bidezkoena ebazpen judizialak betetzea da eta

los autos son decisiones judiciales también pero eso no es el quid de la cuestión de lo que yo le estaba preguntando porque respetar esas decisiones de los tribunales también respetar a los vascos lo que yo le decía que no ha querido usted entrar

respetar a decenas de miles de vascos que han obtenido el respaldo de la justicia

ustedes se revuelven contra los jueces pero en realidad están atacando

a su gobierno lehendakari ante los jueces y parece como que si

eso es lo importante aplicar la ley y tener sensibilidad de país para ustedes a veces es dar la razón a determinado

si ertzainas sanitarios u hosteleros lo mismo da discrepan de su gobierno que tienen que aguantarse porque el gobierno vasco no puede ser cuestionado ni rebatido

a ustedes por lo que ustedes luego comentan y dicen

sé si ese será su nuevo estatus lehendakari el de una justicia subordinada

decenas de miles de vascos pueden ver reconocida su razón por los tribunales en este país afortunadamente para todos ellos

son vascos ejerciendo sus derechos constitucionales lehendakari la justicia ha restablecido los derechos que ustedes

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz si usted se viera o usted o su partido se vieran sometidos a un pleito judicial

usted ha hablado ahora de decisiones antes ha hablado de sentencias reitero un auto no es una sentencia y estamos a la espera de sentencias

grave estamos a la espera de sentencias ha hablado de que ganan estamos a la espera de sentencias señor iturgaiz usted sabe que ni yo ni nadie en nombre del gobierno vasco ha atacado personalmente a ningún juez

el respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales es compatible en democracia con el ejercicio de una crítica razonada y fundada la crítica del gobierno vasco se fundamenta en dos argumentos

en diferentes tribunales autonómicos la lucha contra la pandemia en euskadi se ha desarrollado con menos herramientas y más inseguridad jurídica que en otras comunidades y esta inseguridad

y segundo todas las decisiones que ha adoptado el gobierno vasco se han basado en los dictámenes de una comisión científico técnica que alineada con las autoridades sanitarias

y la evolución de la pandemia el trabajo de científicos y epidemiólogos merece un respeto y su criterio experto de defensa de la salud pública debe tener un valor

y no he conocido otra desautorización de su profesionalidad como la que se produjo en euskadi señor iturgaiz me he negado a judicializar la lucha contra la pandemia primero

cuando ya no tiene utilidad en la pandemia la adopción de medidas ha requerido inmediatez segundo las dilaciones y las contradicciones entre resoluciones judiciales

ha sido una razón para no presentar recursos nolanahi ere

gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejeros

hemos conocido a través de los medios de comunicación los movimientos de su partido para alcanzar el objetivo falaz de un amplio consenso en torno a la futura

pnv y eh bildu ya acercan posturas en materias sensibles como los modelos educativos y la convivencia de educación pública con concertada y privada entendemos que estas primeras conversaciones obedecen a un calendario que surge del propio gobierno que usted conoce y comparte y que a estos movimientos con bildu seguirán otros con otros grupos políticos

para alcanzar ese necesario pacto educativo que dice buscar eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez el gobierno vasco el gobierno vasco lleva tiempo

dialogando para consensuar una nueva ley de educación y sobre la base de los trabajos

hemos considerado posible y conveniente adelantar un año la elaboración del proyecto de ley de educación nuestro objetivo es remitirlo a la cámara el próximo año y será aquí donde se debata

la educación lo es todo es la capacidad para pensar para mejorar para avanzar es pasado presente futuro es visión crítica es responsabilidad es construir país la buena educación es solidaridad es prosperidad es respeto pero también puede ser el caldo de cultivo de la injusticia de la discriminación de los privilegios del odio y del rencor

la igualdad entre españoles y no leyes autonómicas que conforman una amalgama de enfoques y formas de actuar con nuestros jóvenes

españa no necesita una ley vasca de educación por ese motivo pero hablemos de lo que sabemos y que no invita al optimismo todas las personas que estamos en esta cámara eh bildu jamás trabajará por una ley de educación que recoja las necesidades de toda la población de esta comunidad sus objetivos son otros confesados y conocidos parciales y profundamente insolidarios de ahí que sin conocer los detalles de ese acercamiento de posturas pnv eh bildu

la deriva del sistema educativo vasco extremadamente ideologizado y escorado hacia visiones nacionalistas de la historia del futuro y de las lenguas hemos sido testigos de la progresiva eliminación del modelo a una pésima noticia para miles de familias y para miles de jóvenes

además de las derivadas de la obligación de trabajar con una lengua que no es la suya que no manejan bien

porque todos sabemos que esos resultados son mejores cuando en el aprendizaje se utiliza la lengua materna que también en casos determinados es el euskera pero que en el país vasco sigue siendo mayoritariamente el español

por cierto algo que supone una evidente discriminación para las provincias con menor implantación de la lengua vasca aquellas en las que más duelen las políticas de imposición

hasta ahora usted ha defendido esa cohabitación qué piensa hacer ahora

en cualquier caso la nula transparencia con la que ha iniciado este proceso creemos que es muy mal comienzo y ya habrá tiempo además de hablar de los resultados del sistema educativo vasco peores que los de otras comunidades con muchísimos menos recursos eskerrik asko

en el pleno de debate de política general vuelva usted a leer el diario de sesiones y encontrará allí todas las respuestas a sus

en todo caso le diré que en octubre del año dos mil trece hace dos legislaturas aprobábamos el plan heziberri dos mil veinte el marco del modelo educativo pedagógico vasco

elaboramos con la comunidad educativa con la comunidad educativa y con el consejo escolar el documento de acuerdo por la educación con cinco ámbitos de confluencia

convivencia lenguas evaluación y autonomía de los centros y veintiuno bases para el acuerdo y este acuerdo fue remitido a este parlamento y fue aprobado

que comprende aprobar una ley de educación que dé respuesta a los retos de futuro de nuestro sistema educativo

el departamento de educación ha mantenido un diálogo permanente con la comunidad educativa reitero comunidad educativa este diálogo se mantiene

existe una amplia sintonía para avanzar en un pacto educativo hezkuntza hitzarmena la ley de educación vigente cumple veintiocho años todos los grupos parlamentarios han expresado la conveniencia de su actualización y adecuación

también la comunidad educativa reitero comunidad educativa respalda este objetivo ahora bien la anterior ley fue fruto del consenso

por ese motivo el proceso debe ser ordenado y en la medida de lo posible discreto y este es el momento de escuchar a la comunidad educativa de escuchar sus ideas y de escuchar sus propuestas el gobierno está desarrollando esa labor de forma directa con todos los agentes y a continuación sobre la base de

elaboraremos el proyecto de ley que será remitido a esta cámara este será el espacio para el diálogo con los grupos parlamentarios y para avanzar en el máximo consenso posible

y a continuación el consenso legislativo en todo caso y respondiendo

dice usted que la ley de educación está centrada en la imposición de modelos íntegramente en euskera esta afirmación es falsa dice usted que la ley pone en tela de juicio

y también esa afirmación es falsa he dicho que el proceso debe ser ordenado y discreto en lo posible y añado que también

este registro lo formula ante la administración vasca se registra

actuamos con la responsabilidad para cumplir nuestras obligaciones y competencias y desde el respeto a las empresas que realizan esa solicitud el catorce de enero del dos mil veinte emite el gobierno vasco resolución favorable estima la solicitud de abra y se publica en el boletín oficial el veintiocho de enero de dos mil veinte dándose

entre ellas la del consejo regulador de la denominación de origen calificada rioja el diez de marzo del dos mil veintiuno se emitió la resolución del director de calidad e industrias alimentarias del gobierno vasco por la que se emite decisión favorable a la solicitud de protección de dicha denominación y contra esta decisión del veintitrés de abril del veintiuno el consejo regulador interpuso recurso de alzada

el pleno del consejo regulador para tomar en consideración uno de los puntos del orden del día que es la interposición si procede del recurso contencioso administrativo el consejo en aquella reunión decidió

nuestro representante evidentemente votó en contra cada uno sabrá desde su responsabilidad qué votó jaurlaritzak beraz bere eginkizunak argi ditu gai honekiko eta

socialista concha andreu compareció ante los medios de comunicación para expresar su apoyo

trabaja alineado con el consejo regulador y que desde su ejecutivo rechazan la iniciativa de viñedos de álava por su falta de sentido y fundamento pero no hemos venido hoy ni a hablarle de vino ni de viñedos de álava porque en el curso político anterior llegamos a acuerdos importantes con los grupos que sustentan su gobierno

a nuestra posición a pesar de este tímido cambio ha sido ramiro gonzález el único que en contra de lo que ha hecho en múltiples ocasiones ha salido para pedir respeto al proyecto y a su tramitación y calificó de intromisión inaceptable la actitud del gobierno de la rioja es más dijo que se trataba de una politización sin precedentes y que se vinculaba

a un solo territorio quién lo ha consentido pues

porque después nadie ha salido a defender ni los intereses legítimos de las empresas vascas que respaldan el proyecto ni las decisiones tomadas democráticamente en una asociación de la comunidad autónoma vasca ni las que a ese respecto ha tomado el gobierno vasco en el ejercicio de sus competencias

y de forma unilateral ha criticado la legítima decisión de abra y del gobierno vasco de tramitar la solicitud de viñedos de álava y nadie nadie le ha marcado los límites inacción y dejación en la defensa de rioja alavesa que ha sido una constante en los últimos años

han estado ausentes y mudos muchas veces de las que han asistido hau onartezina da

era egokian eta horrela egin dugu no será el gobierno vasco quien vaya a intervenir de manera histriónica en lo que otra comunidad vaya a realizar nosotros defenderemos

los tribunales nuestra actuación porque es nuestra competencia

lo que una serie de bodegas de rioja alavesa quieren llevar adelante porque es su derecho y así lo hemos entendido pero desde luego no vamos a hacer de esto una lucha política

el objetivo de dicho acuerdo en relación al reto demográfico al desarrollar políticas

ayuda a la conciliación desarrollo del envejecimiento activo

y se instaba concretamente al gobierno vasco a la elaboración de un plan interdepartamental

y transversal en relación con el reto demográfico

a las políticas y los programas que se hayan podido poner en marcha por parte de su gobierno en relación a esta relevante cuestión y le preguntamos zein den jarraitu den irizpide

que van a dar una respuesta como gobierno al reto demográfico al problema que tenemos no es un problema nuevo es un problema estructural y en este sentido quiero decirle que nosotros lamentamos que ustedes nos han fallado una vez más no han cumplido sus compromisos usted como lehendakari del gobierno vasco que preside este gobierno

y en esta legislatura es uno de los puntos esenciales del acuerdo de gobierno elaborar un plan interdepartamental en materia de reto demográfico es el compromiso ciento cuarenta pero señor lehendakari es que en el acuerdo al que le he hecho referencia de veintinueve de octubre

mención a que el gobierno vasco en nueve meses tenía que elaborar un plan específico sobre esta cuestión han transcurrido más de nueve meses ha tenido usted además

este plan estamos en septiembre se ha cumplido un año de legislatura yo le voy a recordar algunas cifras pero que usted las tiene que tener muy presentes

que euskadi perdería el veinte por ciento de la población que la natalidad el primer trimestre de dos mil veintiuno respecto al primer trimestre del año pasado ha disminuido un doce coma cinco por ciento

se incrementará un setenta y dos por ciento para dos mil sesenta y uno usted sabe que las matriculaciones

casi un seis por ciento por lo tanto señor lehendakari tenemos

una vez más y destacar la inacción de su gobierno en una materia esencial en una materia crucial en una materia en la que el gobierno que usted preside no puede estar desaparecido y lleva

el veintinueve de octubre pasado es una muestra de la parálisis de su gobierno en los asuntos que deben ser los prioritarios y que deben no solo preocupar sino ocupar al gobierno vasco yo entiendo que ustedes han estado muy

con la pandemia pero esta cuestión no se puede demorar no se puede demorar señor lehendakari porque es que es un asunto crucial importante

ha identificado cinco ejes de actuación apoyo a la emancipación de las personas jóvenes

promoción de la vida autónoma y plena de las personas mayores inserción migratoria y revalorización rural y cada eje contará con iniciativas y actuaciones específicas y esta estrategia se presentará este año agradezco su comprensión con respecto a lo que ha sido nuestra dedicación a la pandemia sí nosotros

la financiación los plazos de ejecución y el sistema de evaluación

estas políticas se plantean como una estrategia compartida sostenida y sostenible en el medio plazo estamos ante un reto de país no un reto de gobierno sino un reto de país

y en el diseño de esta nueva estrategia no partimos de cero las instituciones vascas han desplegado en los últimos años actuaciones con políticas dirigidas a las familias a la conciliación corresponsable al empleo a la vivienda o a la protección social

suscribimos el pacto vasco por las familias y la infancia una hoja de ruta que se materializa en el plan interinstitucional de apoyo a las familias hemos remitido al parlamento el proyecto de ley de juventud y el gazte plana

y este año vamos a contar con un plan de país acordado con el resto de instituciones públicas y en el que van a participar los distintos departamentos del gobierno y este plan otorgará carácter de prioridad a las políticas de apoyo a la autonomía de la juventud

necesitamos un acuerdo de mirada larga que se oriente y concentre en un objetivo central crear las condiciones para que nuestras y nuestros jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo un acuerdo para promover la capacidad de emancipación de nuestra juventud y consecuentemente puedan tener el número de hijas e hijos que deseen

hau da dakigun guztia esto es todo lo que sabemos es decir nada o casi nada pero de ese casi nada

es lógico y es deseable que alguno de ellos sea el de máxima confianza incluso llegando a ser o a convertirse casi en su sombra bueno es algo normal pero lo que no es normal es que esa misma persona sea la que diseñe las encuestas los estudios de opinión que elabora un gobierno sin participación de nadie más porque todas sabemos que esto genera tendencias crean estados de opinión

ni tenga una normativa no es normal que no exista un consejo plural como es habitual en este tipo de organismos inexistente no es imparcial que el asesor personal del lehendakari

no es imparcial cómo formulan esas preguntas y cómo se publican los resultados no es transparente que un centro de estudios de opinión no tenga un plan de trabajo y este sea público que no lo tiene no es transparente que el gabinete no elabore memorias anuales que no las hace no es gobernanza abierta que no tenga ni web propia y que únicamente estén disponibles informes finales sí

no es abierto que este gabinete nunca deba dar explicaciones en sede parlamentaria o en ningún otro lado y ante nadie etcétera etcétera etcétera no cumple

que sostienen al gobierno no han estado a la altura pero ustedes como decía que son miembros

y tienen adquiridos una serie de compromisos en una determinada dirección creo que deben dar pasos y que deben regular este gabinete señora garamendi creo sinceramente que deben ustedes superar como gobierno ese concepto de servicio de información al servicio de los intereses del gobierno para destinarlo al conocimiento y estudio de la realidad vasca o dicho de otra manera tomar medidas para que realmente tengamos un gabinete de prospección sociológica

baja producción renovable aumento del precio de ce o dos aumento del precio del gas analicemos un poco esto hagamos un poco de fact check si vamos

está entrando poca eólica creo que no es verdad sencillamente o sea ha hecho una comparativa de de precios de preponderancia de unas energías sobre otras los últimos cuatro años y no se puede afirmar esto yo creo que sin faltar a la verdad o sea los consumos y he hecho la comparativa de hoy que está marcando el precio el récord el uno de octubre de hoy y de los tres años anteriores y hoy estamos en precios récord y no hay más ni menos consumo el consumo es completamente similar andan los cuatro días de los cuatro años diferentes

una vez descartado lo de que esto es por los consumos altos que no es verdad vamos a la parte de está entrando poca eólica pero es que esto tampoco está funcionando porque por ejemplo hace dos años

que hace dos años utilizando menos gas o la semana pasada

y la eólica estaba metiendo un veinticinco por ciento y estábamos en ciento cuarenta euros el megavatios con lo cual la parte de que hay poco viento tampoco funciona

atribuyen la carestía al aumento del precio del ce o dos y al alto precio del gas y esto es cierto pero es en parte cierto porque es incompleto

explica que la generación de electricidad vía gas sea caro pero no que toda la electricidad sea cara el resto de la electricidad es cara porque pagamos toda la luz al precio de generación vasca

marginalista y sobre esto no le he oído decir nada siendo la clave de todo y usted utiliza todo este argumentario para decir que hay que instalar más renovables aquí pero aquí también hay que ser honestos

que si bien el autoconsumo las comunidades energéticas sí bajan directamente la factura a aquellas personas que las instalen poner parques eólicos sin embargo no abarata la factura

y están pagando lo mismo que nosotros que prácticamente no producimos eólica

así que aquí no sería tanto una cuestión de instalar renovables sino de cuál es el modelo de renovables que instalamos porque de hecho el sistema

de más fuerte penetración renovable y es donde la electricidad está más cara junto con el reino unido y con italia y lo que les une precisamente es la dependencia de los ciclos combinados de gas es decir más ciclos combinados de gas

precios altos y aquí tenemos un problema estructural porque aunque se aumente la penetración renovable si el gas va a seguir siendo la tecnología de respaldo durante mucho tiempo y lo va a ser

y aunque ahora mismo haya un desajuste de oferta y demanda que está por ver si se va a solucionar

no va a ser ni un gas barato por la finitud del recurso ni un ce o dos

sobre el sistema de fijación de precios y también sobre la tremenda sobreexposición al gas que tenemos en este país porque si dependiéramos de nuestra propia generación de electricidad veríamos que estamos en un noventa por ciento expuestos a los precios del gas y hablando de gas también déjeme recordarle que no estoy de acuerdo para nada y creo que es completamente demagógico vincular la carestía

con no estar explotando los recursos de araba y si no explíqueme en qué han abaratado los costes del gas los yacimientos que sí se están explotando en la rioja

unos beneficios escandalosos básicamente

beneficios entre otras cosas especulando con un bien común que es el agua

tan delicado la diferencia entre los costes de generación y venta les están haciendo tener un margen de beneficio

tres cuartos de lo mismo con la nuclear también en manos de tres empresas naturgy

chantajear al gobierno tomando a los consumidores como rehenes

y después con la amenaza del corte de inversión en renovable y usted en vez de salir a defender a los consumidores y a las consumidoras y especialmente a los vulnerables pone el grito en el cielo en favor

que si la seguridad jurídica y tal la seguridad de suministro a precios asequibles como marca la directiva europea dónde está no habla usted de esto usted para quién trabaja en definitiva badirudi ez duzuela asmo handirik neurririk hartzeko hori gero azalduko dut bigarren txandan

lortzera honestidad y verdad cada uno la cuenta como le interesa verdad porque

muchísimas cosas en este gobierno no voy a entrar en ese debate eusko jaurlaritzan eta bereziki

aipatu duzu garrantzitsua dena el tema de la seguridad de suministro seguridad de suministro de todo tipo de energías porque solamente hablamos de algunas cosas y en este caso hemos vivido

intenso en el que hemos hablado solamente el precio de la energía y se nos ha olvidado un tema que usted también suele tratar en muchas ocasiones pero en este caso no se lo he oído comentar

donde se hablaba precisamente que uno de los debates principales era el de la generación de renovables y en definitiva

junto con los precios yo creo que tendríamos que unir los debates y tratarlos de una forma conjunta con una perspectiva única sí es cierto que ambos aspectos están unidos porque si realmente están subiendo

referencia está subiendo el coste de la energía y estamos centrándonos además en energías renovables y el coste del gas que es emisor de ce o dos se está subiendo también pero también porque hay una parte de poca casación en este momento entre oferta y demanda que nos está llevando a sufrir problemas en muchos lugares

en pro de esa acción contra el cambio climático queremos hacer una transición energética muy rápida muy rápida y ello tiene sus consecuencias y una de ellas también es esta que estamos viviendo no es la única razón

la fórmula del coste de la energía no es una cuestión precisamente sencilla y por eso decía que es conveniente abordar esa complejidad de una forma vamos a decir

porque cuando se realiza la reforma de cómo se

no se ha modificado y aquello que era bueno en aquel momento en aquella coyuntura se ha visto que en estos momentos no es lo más adecuado por tanto yo creo que tenemos que hacer esa revisión de una forma

adecuada también en esa seguridad jurídica porque es cierto necesitamos tener una seguridad jurídica que nos permita que los precios de la energía sean adecuados para todos los usuarios y usuarias particulares pero también para el tejido empresarial que en nuestro caso además

y con industria electrointensiva que en este momento está sufriendo

de documentación que se les está enviando en el que se va a cambiar absolutamente la estructura de costes de su energía y que consideramos que no es

y les hacía ser menos competitivos en europa en este momento si además se le aplican unos sobrecostes que desde luego no son aplicables a nuestro juicio

en una tormenta perfecta y la demanda eléctrica el bajón de la

eólica en un determinado momento el que estemos utilizando menos gas el que no queramos nucleares no queremos centrales de carbón

todo eso de una forma conjunta sí está provocando esa tormenta pero no le estamos añadiendo el factor que le estaba diciendo y es que después del parón que hemos sufrido como consecuencia de la pandemia todos los sectores industriales en este momento se están poniendo en funcionamiento todos a la vez y eso provoca que materias primas de todo tipo estemos sufriendo desde luego poca casación entre oferta y demanda y lo estamos sufriendo aquí en mercedes desde luego como un ejemplo claro

en el tema energético y desde luego pentsatzen baldin badugu

askoz ere hobea izango da por tanto estas tres reflexiones relevantes necesitamos más energías renovables sí porque hemos decidido que

no deseamos tener otras fuentes de energía pues hagamos una apuesta por las energías renovables porque de lo contrario

con esos objetivos de más energía más almacenamiento porque si no ese sistema que hemos tenido hasta ahora en base a gas natural

usted mismo decía el gas natural va a seguir siendo importante

es más importante o es y lo he hecho muchas veces en esta tribuna es mejor traer el gas de un lugar tan

de rusia con las amenazas que tenemos o de trinidad y tobago es mejor eso que tenerlo propio pues creo que es algo que también tenemos que debatir de una forma tranquila sin asustarnos

vamos a trabajar por la eficiencia energética y desde luego desde un instrumento como es el ente vasco de la energía que lleva más de cuarenta años trabajando creo que se ha hecho un trabajo intenso sin tener capacidad regulatoria la capacidad regulatoria la tendremos que debatir en otro sitio y coincido que hay que debatirla y hay que dar seguridad

pero el ente vasco de la energía es un instrumento que ha abogado por sustituir carbón y petróleo por gas por la eficiencia energética y por las energías renovables tenemos que continuar en ese camino

directamente el mismo día se convierte en subida de precios para gente en el sistema ibérico por ejemplo portugal no funciona así y eso tiene que ver con el poder de mercado que ejercen

lo que no puede ser es que se esté generando gran hidroeléctrica a seis céntimos de euro

eso no tiene nada que ver con el coste de la transición energética y yo creo que esto usted elude hablar todo el tiempo de esto aquí está la gran pelea de los beneficios de las grandes

sobre lo que se puede hacer y las repercusiones en la economía vasca del fuerte

de la electricidad y la respuesta era literal el gobierno en principio no tiene pensado ninguna actuación en este ámbito así de simple

y tampoco se considera que esa incidencia vaya a ser elevada según un panel tal

del dos por ciento y por eso no hacemos nada es decir la bola de cristal de azpiazu dice

al mercado una vez más porque esto no va a tener consecuencias el mismo día porque no duró ni dos horas la vigencia de esta respuesta de que el ipc iba a andar cerca de las previsiones del banco central europeo salían los datos de ipc

que en un mes cero coma siete por ciento de aumento el interanual en un cuatro por ciento con lo cual una vez más estalla la bola de cristal con la que hace las previsiones este gobierno y con las que decide que no va a intentar intervenir en los precios de la energía insisto aunque reconozco que no es fácil

vendremos con moción después de esto y algunas cosas creemos que se pueden plantear tanto a corto plazo como a medios plazos eta

orduan ba garestiago ordaindu beharra daukagu es como ah se siente no queréis gas se siente a pagar más eta hori ez da egia mesedez

como consecuencia de todo esto y del decreto que se ha establecido en el estado hay unas compañías eléctricas no solo una por cierto que

esos precios que estaban aprobados en unos determinados momentos se cambien e impacten directamente sobre las empresas industriales y eso desde luego en este momento

y eso no es posible y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo eso

forma integral probablemente es una apuesta muy retadora la más retadora que tenemos entre manos y por eso digo que vamos a trabajarla de una forma intensa porque lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer rápido porque esa transición energética

de sistemas de energía renovable también podríamos quizá trabajar en sistemas distribuidos de gas si lo tuviéramos como no lo tenemos ese debate ya ha pasado pero hay que contar todos los aspectos los positivos y los negativos y cuál es nuestra realidad y con la realidad que tenemos pues no tenemos ningún medio que nos permita ser mínimamente autónomos no voy a decir soberanos mínimamente autónomos con pequeños sistemas de generación eólica

lo que usted quiera no vamos a conseguir la energía suficiente pero vamos a trabajarla de una forma intensa para que así sea eso está en nuestras manos y lo tenemos que hacer y ahí le decía que el ente vasco de la energía ha hecho un trabajo y creo que podemos ahondar

necesitamos una estrategia renovable sí una estrategia de eficiencia energética y una estrategia que nos permita tener una postura común en cómo debe ser esa regulación

algo que siendo posibilistas y al mismo tiempo siendo medioambientalmente garantistas entiendo que podemos hacer beraz erronka da erronka potoloa daukagu eta europan

que nos permita seguir adelante pero que nos permita hacerlo de una forma estructurada

y al mismo tiempo lo más rápida posible que no genere incertidumbre ni en la ciudadanía ni en nuestras empresas

que generan energía tener una seguridad suficiente a todos los niveles de grandes instalaciones de pequeñas y de consumo de autoconsumo que nos permitan

cada cinco años eso es lo peor en un sistema de estas características beraz egin dezagun guztion artean eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

sí muchas gracias presidenta buenos días señora consejera consejeros bueno señora tapia usted estuvo a mediados de septiembre en el aniversario del treinta aniversario del sindicato enba y habló habló también

ayer fue un día importante también el consejo asesor de agricultura con las organizaciones profesionales agrarias

una reunión parece que en el tema

señaló en la reunión de ayer que la conferencia del catorce de julio que tuvieron ustedes significaba un punto de no retorno y que desde entonces

para tratar esencialmente los aspectos de la nueva arquitectura ambiental ecoesquemas hay la figura del agricultor activo y etcétera etcétera de agresividad pago retributivo bueno son temas

muy importantes agricultores y ganaderos siete mil doscientos personas seguramente en la comunidad autónoma vasca pero están pendientes de las ayudas de la pac

definición de la negociación se acaba el tiempo nos estamos acercando a fin de año y el trabajo es muy importante europa espera nuestro plan estratégico y por eso yo creo que

en definitiva es importante que las organizaciones agrarias ayer

en relación con cómo está ese plan con asegurar distintas cuestiones que están en el aire y entonces en ese sentido y a día de hoy

de septiembre cómo valora su departamento la situación actual de elaboración del plan estratégico de la pac

el plan muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio efectivamente usted ha citado todas las reuniones que se han producido y alguna bilateral que ha sido importante y dada

concretos que creo que son relevantes para nuestros agricultores y ganaderos en primer lugar hemos defendido desde euskadi como consecuencia de

una región propia porque ello nos posibilitaría una convergencia de nuestros derechos que se pudiera realizar de una forma diferente lo permite así el reglamento pero el ministerio no ha atendido esta petición de región propia y en este sentido a pesar de que no lo compartimos la respuesta que

en cuanto a los derechos que la convergencia de esos derechos en general sea más suave y por tanto haya también limitado las hectáreas elegibles y en nuestro caso suponga

diferentes se ha convergido a veinte regiones distintas y valoramos positivamente por ejemplo que en álava tengamos una región específica para tierras de cultivo de regadío por tanto no hemos conseguido el máximo que pretendíamos pero sí ese aspecto en segundo lugar apostábamos por un beneficiario de ayudas pac

de esta actividad inicialmente el ministerio estaba a favor sin embargo bueno se ha ido modificando y en realidad aquí no ha habido graves

en cuanto al tema de pagos acoplados veníamos defendiendo que se mantuvieran para tener el mayor nivel de ayudas permitido por la comisión y que no se introdujeran muchos subsectores

para el próximo periodo con un crecimiento de un trece por ciento en cuanto a la apuesta de la marcha de los

y que sin embargo como consecuencia de las reuniones que se han producido en septiembre y en concreto de la reunión bilateral que se mantuvo

prácticamente todas las solicitudes se han atendido a la espera de que se vean plasmadas en un documento escrito en la última reunión mantenida se han

en quinto lugar también importante solicitábamos una ampliación de la dotación

hasta el momento tampoco ha sido atendida a pesar de que tenemos necesidades y tenemos capacidad de poder ejecutar más recursos pero continuamos negociando con el gobierno en este sentido

prevemos que en la segunda tercera semana de octubre pueda

presidenta gracias consejera sí usted destacaba en la reunión esa que tuvo con enba en el treinta aniversario

la actual propuesta del ministerio de agricultura y por eso también

sabiendo y conociendo si esa indefinición sigue ahí parece ser que

con esa región pero cómo quedaría en la actual propuesta el conjunto de euskadi los ecoesquemas son elemento esencial

en el sector con lo referido a esos ecoesquemas que sean accesibles que sean aceptables que parece que en este momento es la gran preocupación con prácticas sencillas entendibles realizables y ese es el asunto que las organizaciones profesionales están reclamando y supongo que

también lo harán de la misma manera que las estrategias del pacto verde de la granja a la mesa de biodiversidad el plan

emisiones pueden suponer una reducción de capacidad productiva de españa y hay que ver cómo se gestiona eso con los agricultores y con las

a lo del agricultor activo y a las distintas realidades agrícolas de las comunidades autónomas españolas

también hay dudas sobre la posibilidad de perder recursos en desarrollo rural con este plan estratégico actual no sé cómo estará ese tema o qué noticias tendrá usted pero eso está por ahí y después

en dos mil veintidós y después de lo que están cobrando ahora con el nuevo plan hay muchas dudas en el sector

prevemos segunda tercera semana de octubre pero no tenemos fecha concreta

va bastante rápido pero creemos que vamos a llegar a un acuerdo las regiones productivas con la nueva distribución hemos pasado

tampoco ha quedado mal hubiéramos preferido tener una propia pero en este caso tampoco estamos insatisfechos sobre todo por la parte que corresponde a álava y sí quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la cornisa cantábrica desde las cuatro comunidades en cuanto al establecimiento de ecoesquemas como usted decía los sistemas

que tienen mayor concreción pero estimamos poder llegar en octubre a un acuerdo

andrea usted recordará perfectamente estoy convencido el cierre

de la fábrica de la poderosa multinacional

quedándose en la calle cientos de trabajadoras y trabajadores yo sé que usted lo recuerda yo también quienes tuvimos ocasión de acompañar a los trabajadores

lo recordamos muy bien de ese tiempo a esta parte en los terrenos la multinacional

no desmantelar la industria que allí había no regenerar los terrenos

manteniendo las instalaciones como almacenamiento de chatarra ustedes ahora recientemente han anunciado que han llegado a un acuerdo con esta multinacional por el que les van a transferir siete millónes de euros a través de la sprilur procedente de dinero público a cambio de estos terrenos además la operación

que nos vamos a hacer cargo también de la regeneración

de recursos públicos desde luego a nosotros nos parece que la operación para la multinacional desde luego es una operación muy ventajosa

regalo conociendo los antecedentes de la multinacional sobre todo en la comarca en urola garaia y cómo afectó negativamente esto

a esta comarca pensamos que para la multinacional es una buena operación lo que no sabemos es para nosotros pensamos que una multinacional que dejó en la calle a tanta gente hace tan poco tiempo en esta

de dinero público y además se va a librar de regenerar esos terrenos pensamos que como mínimo la ciudadanía que vamos a pagar a escote esta operación

de aquel cierre tienen que saber exactamente para qué se van a utilizar esos terrenos cuáles son los objetivos que se ha marcado el gobierno a la hora de comprar estos terrenos

instalazio zahar batzuk dauzkana por tanto dado que en estos cinco años esas instalaciones no han sido utilizadas para prácticamente nada alguna pequeña actividad debe haber dentro de los objetivos y los ejes de actuación de sprilur se encuentra desde luego la generación de una oferta de espacios de servicios de actuaciones que permitan zonas previamente utilizadas y que al mismo tiempo nos permita generar esos espacios que puedan dar lugar a nuevas actividades industriales y nuevo empleo desde ese punto de vista se hizo una valoración de ese suelo que es mucho son muchas hectáreas se hizo la valoración del suelo a esa valoración se le restó la actuación que hay que llevar a cabo para sacar a la luz parte de un pequeño riachuelo que circula por ese ámbito y se le restó además

el importe correspondiente a las actuaciones de descontaminación que haya que realizar y a partir de ahí se comenzó a hablar

toda la parcela por el precio correspondiente tal como se lo he comentado creo que es una operación importante y creo que es una operación que va a permitir que

puedan tener actividades distintas puedan tener otros proyectos de desarrollo en estos momentos

también vamos a conocer de forma más detallada de la mano de la diputación foral de gipuzkoa por ejemplo otras actividades que se han acercado

valorización de residuos para tener materiales de segunda utilización en estos momentos u otro tipo de proyectos industriales que requieren

tenemos bastantes escasez en euskadi ese ha sido el objetivo por el cual nos hemos planteado

que por cierto se firma hoy en un contrato privado y a partir de aquí podemos empezar ya a desarrollar todas las actuaciones para que haya actividad industrial novedosa y nueva

sí me ha respondido ustedes no se han planteado unos objetivos concretos en relación al empleo que es la pregunta que les habíamos trasladado

desde luego que es una operación importante a nosotros nos preocupa que la importancia de la operación hasta estos momentos

al cierre de una factoría para ellos después de cerrar esos terrenos

y ahora se los compra el gobierno y se libran digamos de esa obligación de descontaminar

para la compra de terrenos para generar actividad y para generar economía depende también de cómo se haga pero en este caso no es una operación por los antecedentes que tiene y por quién es el actor privado al que se le compran en este caso los terrenos por eso nos parece que era especialmente exigible de cara a la ciudadanía de urola garaia que recibió aquel impacto saber exactamente cuál es el futuro más allá de creo que va a permitir generar industria se han

de esos terrenos y los dos partidos que comparten gobierno han actuado también por su cuenta y ustedes además en esta compra hasta donde nosotros sabemos ni siquiera habían informado al alcalde de zumárraga socio suyo del partido socialista aquí en el gobierno vasco

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidenta andrea el proceso de valoración y de compra se lo

fue la propia empresa la que dijo yo me encargo de hablar con los ayuntamientos de la zona no voy a detallar más puesto que fue así

y creo que ganan con esta operación si nos fijamos en otros emplazamientos similares por la extensión de los terrenos y si hacemos una media general pueden ubicarse alrededor de doce trece empresas y con

podríamos tener algo más de quinientos quinientos quinientos cincuenta empleos en esa

y todo dependerá además del trabajo que haya que hacer desde el punto de vista de ordenación urbana que se tiene que producir ahí de las mejoras en cuanto a infraestructuras de llegada

que permitan que todos los camiones que vayan a circular por allí

con las medias que estamos trabajando esos serían los números con los que estamos barajando conseguir en este momento en ese

que en este momento desde luego no es la mejor en cuanto a emisiones

hitza gracias señora presidenta buenos días a todos señorías señor consejero

preparando una nueva ley de educación que según anunció el lehendakari

se presentará en el parlamento el próximo año una ley en la que toda la comunidad educativa

porque es evidente pensamos nosotros la necesidad de reformar la educación vasca estos días

porque diferentes voces de su partido han dejado ver su predisposición a acordar de forma preferente dicha ley con bildu y esto ha generado una gran preocupación en buena parte de la comunidad educativa conocedora del modelo que defiende esta formación política

y en la desaparición de la red concertada respecto al euskera sabe usted que hemos mantenido aquí en varias ocasiones la postura de que hay que compatibilizar el apoyo al euskera

o no como lengua para la educación durante las últimas décadas el euskera ha sido impuesto por ustedes en nuestro sistema educativo por la vía administrativa consistente en no ofertar

de euskadi dejando a la familia sin libertad real de elección y luego encima

le recordaré algunos datos al respecto que ya hemos expuesto aquí en otras ocasiones en gipuzkoa por ejemplo

y en álava hay dos si una familia que vive en eibar por ejemplo

en el modelo a el centro más cercano está a más de cuarenta y dos kilómetros por la a ocho pagando peajes y a más de una hora y media

o a noventa y ocho kilómetros si vive en tolosa bilbao solo cuenta con tres centros públicos que ofertan el modelo a en infantil

modelo a por tanto no es que no haya demanda por parte de los padres

reiteradamente es que la falta generalizada de oferta hace que muchos de ellos hayan desistido en la práctica

de los padres a elegir el idioma en el que estudian sus hijos

de su departamento de hacer posible esta elección en la práctica ustedes han convertido la posibilidad de matricular a sus hijos en español en una quimera para la gran mayoría de las familias esta manipulación supone desde mi punto de vista un flagrante incumplimiento de la legalidad de la legalidad que usted mismo reconocía y un ejercicio de cinismo impresionante

en una peor calidad de la enseñanza según isei por ejemplo que son datos recientes el trece por ciento de los alumnos de segundo de la eso

ni en euskera ni en castellano y el cuarenta por ciento supera el nivel inicial en castellano

deberíamos avisar por tanto a los padres de que en función de estos datos si su hijo estudia en el modelo quinientos solo tiene un cincuenta por ciento de posibilidades a los trece años

y un diez por ciento de posibilidades de no tener ni siquiera los conocimientos mínimos de euskera y eso repito no lo digo yo lo dicen ustedes por tanto

cómo es posible que adquieran el resto de las competencias necesarias en matemáticas en ciencias y en el resto de asignaturas

es decir ustedes han impuesto por la práctica el euskera en la educación sin importarle su efecto sobre el nivel académico de los alumnos y al hacerlo han hecho un flaco favor al euskera a la vez que han sacrificado la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos

que no solamente no corrige esta situación sino que la agrava y que si hasta ahora la imposición del euskera era de tapadillo por la vía administrativa ahora será descarada y total

y repito nosotros no estamos en contra del euskera sino de la imposición del euskera

y que además se tomen las medidas oportunas para que el aprendizaje del euskera sea efectivo

pero siempre respetando la libertad del que quiere estudiar en español pueda hacerlo con garantías no como hasta ahora

ya ha quedado demostrado que la imposición no funciona y que si persisten en ella

nosotros la vemos como una singularidad positiva de euskadi y una riqueza que hay que mantener en primer lugar porque los centros concertados están cubriendo una demanda importantísima que la red pública no llega a cubrir y en segundo lugar porque su nivel medio de calidad educativa es muy alto y deberíamos estar orgullosos de ello los centros concertados han demostrado en muchos lugares de euskadi ser la última esperanza para aquellos padres que quieren escolarizar a sus hijos en el modelo a

los únicos cinco centros que ofertan modelo a en educación infantil son concertados

y en álava otros dos más es decir los centros concertados están haciendo lo que no hacen ustedes y entiendo que haya a quien le moleste tanto porque están transmitiendo un mensaje muy claro les están diciendo a los padres

pueden hacerlo por eso no les gusta ni a ustedes ni a bildu pero a lo mejor este acercamiento a bildu del que hablan los medios de comunicación no es tal

hoy le quiero dar la posibilidad señor consejero de aclarar cuáles son sus intenciones respecto a estos dos puntos críticos que tienen intranquila como usted sabe a la población y de esa manera

escuchando de primera mano su propia voz muchas gracias eskerrik asko gil jauna

el pasado dieciséis de septiembre la educación es una herramienta clave para nuestro futuro y conscientes de esta responsabilidad como ya conocen y así consta en el calendario legislativo

que dé respuesta a los retos de futuro de nuestro sistema educativo

amplio sobre la definición de lo que tiene que ser la escuela

y al que con usted también en su momento tuve la oportunidad de hablar porque entiendo que se lo debemos a la sociedad se lo debemos a la comunidad educativa y se lo debemos también a los agentes

la sociedad vasca es consciente de que sobre todo con la educación nos estamos jugando el presente y sobre todo nos estamos jugando el futuro del país más allá de cuestiones más ligadas a legítimos intereses partidarios los responsables políticos debemos responder con un acuerdo educativo de fondo un pacto que recoja lo mejor de lo que nos exige la sociedad lo que demandan los profesionales

los sectores educativos debemos ser capaces de definir un nuevo marco que permita tomar en consideración las aportaciones de las personas expertas

como sujeto activo de su aprendizaje y a las familias y al profesorado como instituciones capaces de guiar y acompañar

y esta es una cuestión clave un nuevo marco que nos permita configurar una organización escolar coherente con los objetivos y trabajar para implantar un modelo de gobernanza del siglo veintiuno para el conjunto del sistema educativo vasco

el talante positivo que la mayoría de representantes de los diversos grupos políticos de esta cámara mostraron durante el debate de política general

la reiteración de sus planteamientos de sus preguntas e interpelaciones

si su pretensión es generar confusión a la ciudadanía y se lo aseguro no lo va a conseguir se empeña usted en debatir sobre

y en este caso la libertad de elección de las familias y los modelos educativos

el resultado de la proposición no de ley registrada por su grupo sobre la defensa de la libertad de elección de modelo lingüístico en la educación

por los grupos nacionalistas vascos eh bildu socialistas vascos elkarrekin podemos izquierda unida esto es un acuerdo de todos los grupos

por si lo ha olvidado le recuerdo lo acordado por esta cámara y cito textualmente avanzar hacia un sistema educativo plurilingüe con el euskera como eje central

las actividades para la mejora de su conocimiento en el alumnado

no hay duda en torno a la libertad de elección de las familias no hay duda y así se recoge en el marco actual de nuestra ley de escuela pública vasca en sus artículos cinco veintiuno cincuenta y dos

desde su aprobación hace veintiocho años este gobierno ha trabajado trabaja y trabajará

conforme al marco legal vigente y en eso no hay duda en el marco de la nueva ley de educación el sistema educativo vasco debe seguir apostando por ayudar al alumnado en su desarrollo como personas con perfil multicultural y plurilingüe de forma que se integren en un mundo global se comprometan con el uso activo del euskera conozcan la cultura vasca y al mismo tiempo

no hay duda ningún grupo en esta cámara tiene duda

tampoco hay debate en algo que me cuestiona que es

adecuándose a la diversidad sociolingüística que existe en euskadi y daría margen a las familias para optar por uno u otro modelo debemos fijar en todo caso unas nuevas reglas de juego de forma que se incorporen nuevos compromisos que la sociedad nos demanda no solo en el ámbito sociolingüístico sino también

no sé no la tendrá usted de las dudas nosotros las tenemos y miles de familias también las tienen existen

pero que hay miles de familias que tienen dificultades para elegir

en un modelo en el modelo en español es evidente

la ley obliga a que sea así pero no se está cumpliendo en la realidad práctica y ahí están los datos de los diferentes centros dice usted que el único objetivo de que yo plantee estas cosas aquí es generar confusión en la ciudadanía

no hemos sido nosotros los que hemos generado noticias a este respecto

nuestro objetivo es justamente lo contrario clarificar la situación por la preocupación

que este tipo de declaraciones han generado en la ciudadanía y eso

más que leerla y bueno me tranquiliza mucho que usted ahora no haya hablado

sino de amplio acuerdo me alegro de que esté usted dispuesto a hacerlo así yo también quiero puntualizar

pero bueno no pasa nada todavía tenemos tiempo espero que tengamos la oportunidad de hacerlo porque como sabe nuestro modelo incorpora algunas cuestiones que ya sé que no estarán muy cómodas

pero son representan una parte de la sociedad vasca también y me alegra oírle decir

en la letra pequeña esperemos que esto luego efectivamente sea así en todo caso quiero desde aquí aprovechar para ofrecerles nuestra colaboración como no puede ser de otra manera

creemos que es necesaria nos gustaría efectivamente que fuesen las cosas como usted dice

con un amplio acuerdo y que efectivamente respondiese a la pluralidad de la sociedad vasca

y en ese sentido reitero mi disposición mi mano tendida mi colaboración

gil jauna como le he indicado en mi anterior intervención

es un derecho que las familias ejercen de manera consciente y responsable y así seguirá siendo otra cuestión es que no se corresponda con las ideas que cada uno de nosotros podamos tener pero son las familias

el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se ejercen por medio de la elección de centro en el marco de la oferta educativa gurasoek

familiek askatasun osoz hala aukeratuta conocida esta realidad inapelable

de actitud y lo que le propongo es le propongo la conveniencia de adaptar su discurso a la realidad de una voluntad y decisión de las familias vascas le propongo que abandone el intento vano

le propongo dejar de cuestionar un derecho que se está ejerciendo desde hace veintiocho años

le propongo que abandone el intento vano de confundir y asustar a la ciudadanía acerca del futuro de la red concertada le propongo que abandone el intento

y le propongo en definitiva un cambio de actitud en favor de la educación y las familias desde la asunción de la realidad auténtica gure

estamos para escuchar debatir y tomar en consideración las aportaciones de las personas expertas en materia de educación nire

egoki dezakegu gure hezkuntza eskaintza gure hezkuntza elkartearen eskarietara la sociedad vasca es muy consciente de que sobre todo con la educación nos jugamos el presente y el futuro del país y por eso las y los responsables políticos

de fondo un pacto que recoja las demandas que nos plantea la sociedad las y los profesionales y los sectores educativos y en estos momentos es el momento de ellos de los técnicos de los profesionales de los agentes educativos de las comunidades escolares

nuestro momento es del de escuchar porque todo ese acuerdo educativo tendrá que venir aquí

a esta cámara para reflexionar para escuchar que nos hablen pero que escuchemos sin prejuicios sin ideas preconcebidas

por lo tanto ahora se trata de escuchar a la comunidad educativa

una actitud abierta al diálogo y al encuentro tal como le he dicho

y los profesionales de la educación a los y las directoras de los centros respuestas tardías respuestas que cuesta mucho gestionarlas

comienzo por subrayar que no ha habido cambios en el modelo de atención telefónica en los procesos de interacción con la ciudadanía este modelo de atención se enmarca en el modelo general del servicio de atención a la ciudadanía y utiliza los canales de atención establecidos para todo el gobierno como son el de internet el telefónico el presencial

no obstante y usted debe de saberlo porque lo hicimos con absoluta transparencia el pasado dieciséis de septiembre se pidió a los equipos directivos

esta solicitud tiene un contexto que la justifica la complejidad que desde el punto de vista de gestión

esta solicitud responde a un objetivo que también la justifica se trata de recoger convenientemente todas las peticiones priorizarlas y poder gestionarlas de la manera más adecuada

beti beti hobetu beharra dago eta beti saiatuko gara horrela hobetzen pero como le he indicado la complejidad que supone el inicio de curso

analizar y priorizar convenientemente todas las incidencias y necesidades de todos los centros es de justicia primero reconocer el trabajo de gestión de los equipos del área de personal de las delegaciones y de la dirección de gestión de personal durante los meses de agosto

y a quienes además quiero aprovechar este momento para agradecer la implicación y el gran trabajo

sábados y cualquier día a partir de septiembre se han provisto los refuerzos profesionales covid de acuerdo a las necesidades de los centros educativos un dato

esto supone un incremento del diecisiete coma tres por ciento hemos pasado de mil sesenta y cuatro profesionales el curso pasado

eskaini gabeko erretiroak aldi baterako etenaldiak eta abar a partir del siete de septiembre se inicia el procedimiento ordinario de cobertura de sustituciones y otro dato

desde el día ocho hasta el veintitrés de septiembre se han gestionado en quince días cinco mil catorce sustituciones cinco mil catorce sustituciones en dos semanas

y esto también nos tiene que dar qué pensar plaza horietan mota guztietako kasuistikak sartzen dira aldi baterako ezintasunagatiko arrisku bajak eszedentziak

me pregunta usted si creo que la opción de la consulta berlinesa supone la expropiación a propietarios de más tres mil viviendas fondos de inversión y empresas inmobiliarias fundamentalmente

es adecuada para ampliar el parque de vivienda de alquiler social pero

o el de euskadi sobre la iniciativa berlinesa le diré que se trata de una propuesta extrema

que uno no es vinculante dos al margen de su encaje jurídico

si hiciéramos una cuenta sencilla de una media de cien mil euros por vivienda estaríamos hablando de veinticuatro mil millónes

y tres no está respaldada porque ningún partido alemán a excepción

de los votos así que estaremos atentos a su recorrido

es universal pero las iniciativas para intentar paliar sus efectos no se pueden trasladar miméticamente las realidades de cada territorio

y requieren el desarrollo de políticas de vivienda específicas y adaptadas a esa realidad sabe cuál sería la consecuencia práctica de aplicar la propuesta de berlín en euskadi

para empezar el ochenta y cinco por ciento de la población de berlín vive en alquiler y el parque de vivienda está concentrado en unos pocos operadores mientras que en euskadi ese porcentaje es algo más del doce por ciento y sus propietarios son en gran mayoría particulares

o por la herencia de sus padres como le digo las empresas que operan en berlín

de hecho esta iniciativa cuyo objetivo es expropiar a grandes fondos lleva el nombre de uno de ellos propietario de más de cien mil pisos

en muchas ocasiones que no hay fórmulas mágicas para acabar con el problema de la vivienda en euskadi desarrollamos una política de vivienda integral con medidas que actúan simultáneamente

la captación de vivienda vacía un sistema amplio de prestaciones económicas la compra de viviendas a terceros que efectivamente también lo hacemos o la adquisición de vivienda a través del derecho de tanteo y retracto que por supuesto

cuando lo consideramos necesario todo ello hace

de las viviendas alquiladas en euskadi las personas y familias arrendatarias con algún tipo de ayuda pública y que nos hayamos convertido en un referente para el resto de territorios por nuestra amplia cobertura social en esta materia pero también somos conscientes de que las necesidades son todavía muchas

nuevas fórmulas que nos permitan mejorar el acceso de la ciudadanía

y efectivamente tenemos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y dos demandantes

una vivienda pública en alquiler pero también hay que decir que el sesenta y ocho coma cinco por ciento de esos demandantes

ya están residiendo a día de hoy en viviendas en alquiler y que la mayoría de ellos un porcentaje muy alto reciben ayudas del gobierno vasco
para el pago de ese alquiler eskerrik asko

una iniciativa nuestra de incorporar el interés superior del menor en todas las políticas públicas y en todas las actuaciones de la administración pública nuestra compañera tinixara guanche comenzó citando a eduardo galeano en una cita que quiero recordar

se niega a los niños el derecho de ser niños el mundo trata a los niños pobres como si fueran basura el mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero

a los que no son ni pobres ni ricos el mundo los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano

y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños agian galdetzen dute zergatik planteatzen dugun interpelazio hau bada

los datos del informe al que haré referencia son de la última encuesta de pobreza y desigualdades sociales de dos mil veinte realizada durante el pasado verano por el órgano estadístico de su departamento

la pobreza infantil ha aumentado un punto y medio en dos años para alcanzar a un once coma siete por ciento de la población menor de catorce años la tasa más alta desde dos mil ocho estamos solo ante el principio de lo que van a ser las consecuencias socioeconómicas de esta crisis

de dos mil veinte deben leerse con precaución pero también con valentía porque algunos son muy duros e interpelados e interpretados con voluntad política de cambio

indicador ha mejorado desde entonces ni se ha recuperado en este sentido aunque ustedes intentan hacer progresión de datos desde dos mil dieciséis o dos mil dieciocho

desde dos mil ocho no se ha mejorado ni en pobreza ni en desigualdad es más en esto último y según la encuesta ha aumentado hasta los niveles de hace veinticinco años la pobreza también crece en las familias monomarentales decía usted en unas declaraciones confiamos que los próximos cambios legislativos mejoren la atención a los menores de esos colectivos más desfavorables pero parcelar los datos de pobreza solo sirve cuando queremos centrarnos en las ramas y evitar ver el bosque

dos mil treinta que todas hemos asumido es el aumento de la natalidad pero en sus políticas vemos que ustedes no entran a las causas estructurales que hacen que tener hijos o hijas en euskadi sea un factor de empobrecimiento ni analizan que estamos haciendo mal para que niños y niñas sufran de forma más grave los impactos de las crisis que nosotros

berez egin dezakeela zerbait gure ikuspuntutik ez y se podrían estar preparando otro tipo de medidas

con ayudas a la conciliación sin pérdida de poder adquisitivo o de apoyo para incrementar su capacidad adquisitiva incluso otras orientadas al bienestar de la infancia y la adolescencia con medidas como acompasamiento de los tiempos de los niños y niñas y las familias vacaciones horarios

espezifikorik nos preocupa que lo ocultemos y que lo normalicemos porque aquí señora artolazabal no todo va bien y no va bien

de pobreza severa a pesar de ser atendidas por prestaciones sociales ustedes no van a la raíz

que están en pobreza severa la pobreza severa tiene rostro infantil y convive en un hogar familiar especialmente en hogares monomarentales uno de cada cinco pero también en hogares con familias numerosas el diecinueve por ciento un dieciocho por ciento de familias en situación de pobreza con hijos e hijas a cargo ha tenido problemas para pagar servicios básicos como la electricidad el teléfono o el agua además

su consumo energético y el uso de la calefacción y lo más grave es que hay niños y niñas que han reconocido haber pasado hambre pasado hambre en euskadi

handiegia porque cuál es el nivel soportable de pobreza cuánto tiempo es el deseable que estas personas se mantengan en esta situación

y la pobreza se transmite de generación en generación y el ascensor

y no podemos asumir que haya pobreza y desigualdad pero este es el resultado de un modelo es el resultado de un modelo de país un modelo que al parecer no interesa cambiar para algunas y para algunos y aunque sean ustedes expertas en la selección de datos y en el llamado

los datos demuestran que el sistema de protección social vasco se queda corto para acabar con la pobreza que se crean empleos basura que se sigue

a la precariedad y a la pobreza y deben entender que me imagino que así lo entienden que detrás de estos datos hay personas

cronifica la vulneración de derechos humanos de niños y niñas y condiciona su futuro todos los organismos especializados en la lucha contra la pobreza

alertan que la vuelta a la normalidad luego nunca va a ser igual para todas

pero en este momento menos no dejemos que las niñas y niños estén o puedan estar entre las principales víctimas de la covid y sin haberse contagiado

el ochenta por ciento de los niños y niñas que viven en pobreza serán

y es necesario que estas desigualdades se corrijan cuanto antes a través de políticas públicas acabando con la segregación escolar y mejorar su situación es voluntad e inversión pública somos conscientes de los impactos positivos que han tenido

pero desde la prudencia porque han sido políticas temporales ustedes así lo han defendido y porque ha servido para la urgencia lo que está por demostrar es que sea la senda por la que paliar los efectos de esta crisis porque tenían la previsión de llegar a diez mil personas

que les trasladamos cuáles son las intenciones de su departamento señora artolazabal ante el repunte de pobreza infantil experimentado en euskadi

con usted compartimos preocupaciones aunque a veces en la mayoría de las veces discrepamos de nuestras percepciones de la realidad y en este caso

tal y como usted reconoce el nivel de bienestar de la sociedad vasca está por encima de un noventa coma seis por ciento

de su coalición y permítame pensar que en este dato algo tendrá que ver el trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años en materia de protección social y lucha contra la pobreza me reconocerá también que los datos de la última encuesta en euskadi son francamente buenos y no me negará que si los comparamos con otras comunidades autónomas son todavía mejores le agradezco que lo reconozca pero también comparto con usted que no podemos quedarnos ahí y que es muy importante seguir avanzando en la cohesión social es clave prevenir y atajar las desigualdades poniéndolo en el centro a las personas

y en esta tarea de avanzar en cohesión social teníamos ya detectada la mayor situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las familias con menores a su cargo los resultados de la última encuesta de pobreza y desigualdades nos confirman que los indicadores de pobreza en estas familias se mantienen estables sin mejorar

este indicador siempre es superior en familias con menores que en familias sin menores y las situaciones de pobreza real en dos mil veinte afectan a uno coma ocho unidades familiares

a cuatro coma ocho familias con menores y a quince coma seis familias monoparentales es por eso

e invertir más en las personas la lucha contra la pobreza infantil debe encuadrarse necesariamente en una estrategia más amplia de garantía de derechos y oportunidades de niñas de niños y adolescentes buscando la igualdad de resultados asegurando un tratamiento diferenciado de las familias monomarentales en materia de garantía de ingresos que brinde un punto de partida adecuado a sus hijos e hijas

asegurando una base desde la que construir oportunidades y prevenir la reproducción de la pobreza revisando cada vez que sea preciso

nuestro futuro está directamente relacionado con las oportunidades de las mujeres de quienes vienen a trabajar y a vivir a euskadi de las jóvenes

del desarrollo de su talento sus capacidades y su participación social como venimos reconociendo la edad el origen y el género siguen siendo factores de desigualdad más aún cuando estos perfiles se cruzan como en las familias monoparentales con hijos e hijas a cargo más aún

afectan en mayor medida las situaciones de pobreza infantil somos conscientes de la necesidad de articular políticas de protección a los colectivos más vulnerables por las que debemos seguir trabajando para evitar que caigan en situación de pobreza extrema y en ello estamos quiero recordarles las ayudas de emergencia social que tienen como objetivo cubrir

se utilizan como recurso paliativo que evita situaciones que pueden conllevar privaciones y carencias de primera necesidad y más en los casos de unidades convivenciales donde hay menores las cuantías destinadas a esta medida de protección han sido en los últimos años veintisiete millónes y medio de euros anuales sin tener en cuenta

pusimos en marcha y en el caso de las unidades convivenciales con menores a cargo las cifras en el último año

por otro lado anualmente se habilita una partida de cuatrocientos mil euros para luchar contra la pobreza en lo referente a las ayudas por el pago del suministro eléctrico y de las cerca de siete mil ayudas gestionadas en este concepto

un porcentaje muy importante ha sido destinado a familias en situación de extrema vulnerabilidad y con menores a cargo en el marco de las políticas de apoyo a las familias desde dos mil doce

y su aplicación permite dar un trato más equitativo a los distintos tipos y situaciones familiares este sistema es aplicado tanto en las ayudas a familias con hijos o con hijas a cargo como en las ayudas a conciliación incrementándose estas últimas ayudas en el último año en un treinta por ciento en el caso de familias monomarentales familias numerosas familias con algún miembro con discapacidad o en las que alguna de las personas que la compongan

mejora en el tratamiento de las unidades familiares con personas menores de edad a cargo en el marco del sistema vasco de garantía de ingresos en este caso

y creo que también la responsabilidad de los grupos de esta cámara para no tramitar esa ley que podía haber evitado que hubiesemos perdido los dos años que hemos perdido para atender a estas

tendremos que ver por qué no se pudo tramitar esa ley verdad mejora gradual de las prestaciones económicas por hijos e hijas a cargo se ha ampliado esta ayuda de dos a tres anualidades hemos desarrollado medidas de acceso a las haurreskolak de las familias con rentas más bajas y así a partir del año dos mil diecinueve quedan exentas de las tarifas aquellas familias

y hemos desarrollado también un programa piloto de atención infantil en situaciones de especial necesidad

servicio de atención integral a familias monomarentales a través de la asociación alavesa de trabajo social

a acción familiar euskadi y tampoco podemos olvidar que con la llegada del covid

de nuestro país de manera inmediata pusimos en marcha como usted ha dicho el programa azken sarea indartzen destinado principalmente a familias con hijos e hijas

desprotección económica problemas de vivienda aislamiento social desvinculación y falta de habilidades personales y red de apoyo para realizar labores de cuidado de menores que estén a su cargo

han sido destinadas a familias que en su mayoría contaban con menores y en la misma línea aumentamos también las ayudas destinadas a las aes

como en dos mil veintiuno con otros quince millónes de euros adicionales quiero recordarle también el programa aukerak suspertzen que pusimos en marcha durante el confinamiento

como sabe se trata de un programa de apoyo educativo comunitario destinado a niños y niñas y adolescentes en situación de desventaja social que están cursando estudios

y su objetivo es que puedan continuar con el proceso educativo

adolescentes y sus familias para participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje

y adquirir o reforzar habilidades parentales en este ámbito

se están consolidando y se van a mantener en los próximos presupuestos atendemos a mil doscientos setenta y cuatro menores con la participación de más de una veintena de entidades del tercer sector social y cabe subrayar

como le decía vamos a seguir trabajando adaptando nuestros programas a las necesidades sociales para evitar que las familias en general y las familias con menores a cargo en particular

de medidas y ayudas implementadas pero es que el aumento de la desigualdad aunque solo sea experimentado por un diez por ciento de la población vasca significa que hay vecinos

o pagar el alquiler y de niños y niñas que se ven profundamente afectadas por la vulnerabilidad y precariedad del hogar en el que viven beharrezkoa da

en el tipo de políticas y que vamos a ser meras gestoras de la pobreza sin poner la atención sobre la cronificación de esta y sobre el aumento de la brecha de la desigualdad para nosotras esto no es admisible para un gobierno que apuesta por los derechos humanos de la infancia como eje central de sus políticas no es aceptable que rebajemos las metas a las que aspiramos con la excusa de que no se puede llegar a todo el mundo tampoco es admisible no ofrecer soluciones integrales no coordinar políticas y enfoques porque no solo

sino la calidad de la vida que tiene hablamos de intervenir en materia de educación de salud de vivienda o de erradicar la pobreza energética

en situación de pobreza severa coinciden con niños y niñas afectadas por la segregación escolar por las tasas de concentración del sistema educativo con aquellas cuyas familias sufren más la brecha digital con quienes viven en familias que tienen que elegir o poner la calefacción no podemos seguir poniendo parches además es que no son suficientes pasamos la pelota de una administración a otra y además muchas personas se quedan fuera del sistema por no responder a perfiles

que no atienden a la cronificación de la pobreza que no trabajan en la prevención y solo sirven para paliar golpes

empleó cuando presentó la encuesta es necesario acabar con la normalidad de la pobreza infantil y es necesario romper

a la pobreza durante toda su vida simplemente por haber nacido en una determinada familia es tan injusto como arbitrario en varias ocasiones

traído propuestas de cómo construir mimbres de otra manera por ejemplo incorporando el interés superior del menor a las políticas pero de forma real y así no estaríamos hablando de las críticas que lanbide y sus criterios de interpretación han recibido y reciben por privar a menores o a las unidades convivenciales en las que habitan del apoyo económico

tienen a nuestro juicio por delante cuatro escenarios o marcos de políticas públicas que entendemos no están lo suficientemente aprovechados para impulsar reformas sustanciales por un lado los fondos

la ley de educación que actualmente es segregadora en parte debido a la concertación y la ley de infancia en los fondos next la infancia no puede pasar desapercibida

y eso solo se hace con incremento de las rentas familiares y del sistema de protección social infantil con mejora de la equidad en la educación con la mejora de la atención sanitaria

que son necesarias para vivir techo digno alimentación digna entorno digno señora artolazabal una estrategia de lucha contra la pobreza infantil que aborde de manera integral lo que necesitamos cambiar sabemos que la infancia nos importa a todas nos importan nuestros programas y en nuestros discursos y también
real y en la vida cotidiana ahora tomémonoslo en serio eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea artolazabal andrea zurea da hitza

la situación de desigualdad que se está produciendo creemos que es algo en lo que ya venimos trabajando pero que tenemos que seguir incidiendo pero bueno yo creo que la situación en la que nos encontramos que es una situación comparada con otras realidades de clara

sino porque ya venimos trabajando durante hace muchos años más de treinta años en esta sociedad en este país venimos trabajando en materia de protección a las personas más vulnerables y usted cita una serie de leyes y retos pero es que el gobierno ya está trabajando en ello en la ley de educación se está trabajando en los fondos

un anteproyecto de ley me gustaría que ustedes también en esta ocasión aprobaran mejoras en esa ley para que pudiera entrar cuanto antes en vigor

ayudar a esas familias que ya desde el año dos mil dieciocho que se presentó la proposición de ley por parte de los grupos que sustentan a este gobierno no tuvo el éxito

estuvieran mejor protegidas los datos de la encuesta demuestran que a pesar de que la incertidumbre de estos meses han sido altos

por todas las políticas que todas las instituciones vascas hemos puesto encima de la mesa para ayudar a estas personas que peor lo están pasando aunque somos conscientes que de verdad las familias que tienen hijos e hijas a cargo tienen mayores dificultades

usted y yo creemos una sociedad más justa que sea más que esté más cohesionada y además que tenga más

pero eso requiere de medidas concretas y yo ya le he señalado algunas y también le voy a señalar ahora algunas más en las que estamos desde el departamento estamos trabajando

estamos trabajando en el diseño de un programa de garantía infantil que integra la lucha contra la pobreza infantil en un marco más amplio de garantía de derechos e igualdad de oportunidades

programa que va a estar alineado con la estrategia de la unión europea y que va a incluir diversas áreas transversales como van a ser la inclusión social económica salud educación el combate contra la violencia contra los niños y niñas su garantía y la protección de ellos el apoyo y la protección en global a la infancia

y por tanto creemos que es un marco necesario transversal que nuestro departamento en este momento con la dimensión que tiene puede afrontarlo con garantía

ya el cuatro de junio el consejo de la unión europea estableció una garantía estableció o recomendó en la creación de una garantía infantil europea que queremos impulsar desde nuestro contexto a través de ese programa que como le digo a partir del año que viene vamos a empezar a trabajar algunos datos en euskadi estamos en un trece por ciento de pobreza infantil cuando la media del estado español es el veintinueve coma cinco por ciento y el de la unión europea del veintiocho por ciento y estos son datos

de políticas sociales de los cuales ustedes son responsables podemos afirmar y lo firmamos con rotundidad que esta diferencia se fundamenta por el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social que a través de sus herramientas principales como son la rgi y las ayudas de emergencia social

ayuda a las personas y a las familias que necesitan de verdad

la proposición de ley presentada en el dos mil dieciocho estaríamos en otra situación ahora tenemos la oportunidad de corregir esa situación con el nuevo anteproyecto de ley en el que se está trabajando y antes de finalizar yo sí quisiera tenderle la mano para que en las próximas semanas

y me parece que es una magnífica oportunidad para que podamos compartir
resultados y apoyos y poder ayudar realmente a la infancia de este país mila esker eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamazazpigarren

gordillo jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señora artolazabal esta mañana tengo entendido que ha
estado usted en un acto solemne representando el traspaso

traspaso de las competencias en materia de prisiones y me preguntaba si nos podría aclarar aquí en sede parlamentaria

que van a tener los funcionarios transferidos habida cuenta que hemos leído en prensa que esta semana se ha estado negociando se ha reunido usted con los sindicatos

pensado el gobierno aprobar la rpt la relación de los puestos de trabajo si se va a mantener por ejemplo la posibilidad de que los funcionarios soliciten una prórroga en la edad de jubilación

es verdad que fueron a negociar con los sindicatos con traductores en euskera gracias señora presidenta eskerrik asko gordillo jauna

de los funcionarios de prisiones se van a mantener y se van a mejorar y la verdad

se lo digo me ofende el que me pregunte si realmente

con traductores dando por hecho que nosotros utilizamos el euskera como un arma arrojadiza que parece que es lo que usted hace siempre que tiene oportunidad cuando no tiene otra serie de argumentos para poder criticar la acción del gobierno de verdad me parece lamentable

creo sinceramente que hoy es un día histórico en el que por fin después de cuarenta años se ha cumplido con una ley orgánica relacionada con una transferencia tan sensible e importante como es la de instituciones penitenciarias que lo que viene es a mejorar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de libertad y que creo que en eso

de los funcionarios de prisiones se van a mantener y en ocasiones se van a mejorar eskerrik asko eskerrik asko artolazabal andrea

y eso que el grupo podemos les aprueba prácticamente todo lo que presentan ustedes en general y concretamente en temas de prisiones

amable en el debate pero veo que no es solo con ella que también es conmigo

a ver si me las puede contestar porque estamos en sede parlamentaria esta mañana creo que en el acto que ha presidido usted no ha aceptado preguntas de periodistas

mire leo en la nota de prensa que su equipo ha distribuido que han entregado tres manuales de trabajo

directores las directoras de las prisiones el primero es un manual de régimen interior y seguridad donde se apuesta por medidas de carácter terapéutico y educativo qué pasa hasta ahora se maltrataba a los presos el segundo un manual de gestión penitenciaria

el tercero un manual de intervención penitenciaria en el que se recopilan los actuales programas

no había reinserción hasta ahora no hay reinserción en el régimen común acaso mire señora artolazabal yo no sé usted que ha sido directora financiera de osakidetza imagínese que cambia de jefe y llega el nuevo jefe y le dice artolazabal aquí tiene usted el plan general de contabilidad

yo lo que creo sinceramente señora consejera es que aquí en esta cuestión han entrado como un elefante en una cacharrería en el tema de personal en el tema de las transferencias esta mañana decía el lehendakari que ha sido un traspaso tranquilo

por los símbolos mucha prisa por poner el símbolo del gobierno vasco el lunes quitar el escudo de españa en fin parece que le molestaba he visto mucha prisa por aprobar una ley

lo que nos presenta y luego además por cierto en aukerak que lo ha mencionado usted también creo que esta mañana en las declaraciones que ha hecho

a treinta y nueve personas en fin yo lo que veo señora consejera y simplemente esto servirá para anunciarle que en tema de prisiones parece que tendremos

muchos debates y mucho diálogo yo creo que aquí el gobierno vasco tiene todavía mucho por hacer y mucho que aclarar porque con esto termino simplemente yo creo que antes de verdad

sobre cómo hacer su trabajo yo creo que es conveniente analizar el sistema que hay efectivamente

evaluarlo y a partir de ahí proponer las medidas que se crean pertinentes pero una vez que se conozca el sistema y no entrar directamente como un elefante en una cacharrería

eskerrik asko gordillo jauna artolazabal andrea zurea da hitza usted me preguntaba por las condiciones
actuales del traspaso en materia de los medios materiales y personales y ha hecho una intervención

nosotros no hemos entrado como elefante en cacharrería

hemos trabajado con los funcionarios y los responsables tanto del ministerio de interior como los actuales responsables de las cárceles y de los centros penitenciarios lo hemos hecho de una forma sosegada tranquila y lo vamos a seguir haciendo con esa forma no le voy a entrar a responder

nosotros defendemos el autogobierno creo que hemos tardado cuarenta años en que se cumpla una parte muy importante de este autogobierno y creo que vamos a demostrar

en relación a las condiciones laborales y centrándome en la pregunta decirle que hemos llegado a un acuerdo con

que es la central sindical con mayor representación en el ámbito de las prisiones vascas

en la mesa sectorial de la administración general y que se trata de un acuerdo prudente que ha sido enriquecido con las aportaciones de los sindicatos presentes en la mesa sectorial

esto significa que tenemos dos años para seguir negociando y perfilando los puestos de trabajo en los centros penitenciarios esa rpt que tenemos que hacer y en este sentido

que el capítulo de permisos especialmente importante para el personal de prisiones ya que disfrutan de algunas concesiones que no tienen compañeros

y en materia retributiva otro aspecto importante de las negociaciones es el acuerdo que garantiza que la plantilla perciba el salario de los niveles mínimos de la administración vasca lo que

al resto del personal por su parte se le mantendrá recogido en el momento de la transferencia y en el capítulo de antigüedad también decirle

la nómina de toda la plantilla se verá incrementada en este capítulo

a los términos de la administración de justicia vasca y ello supondrá de inicio una mejora salarial de todas las nóminas en el capítulo de vivienda se asumen las obligaciones respecto al disfrute de su uso en los centros penitenciarios de manera que se irán prescindiendo a medida que venzan los acuerdos firmados con anterioridad

y trabajadoras su condición de socio protector o protectora

agirre andrea zurea da hitza gracias señora presidenta buenas tardes a todas y todos y buenas tardes señor zupiria